de manera breve

proyecto de ley municipal presentado por el grupo socialista

esta comunidad y en concreto los ciudadanos vascos necesitan tener cuanto antes una ley municipal

la mejor ley municipal posible y pensamos que este proyecto de ley presentado por el grupo socialista aunque mejorable obviamente debería

para que a partir de ese proyecto el resto de grupos políticos

en forma de las enmiendas que ellos consideren para como digo tener la mejor ley municipal en euskadi que buena falta nos hace después de treinta años y siendo como todos ustedes saben la única comunidad autónoma de españa que sigue sin tener una ley municipal creo como digo que este proyecto de ley podría ser una buena base para que todos cuanto antes nos pongamos a trabajar sobre ella y de ahí nuestro voto a favor de la toma en consideración

superó todos los trámites necesarios y por lo tanto creo que en lugar de posponer nuevamente este debate

a próximos años lo que se necesita es que se tome en consideración y a partir de ahí cuanto antes con el trabajo de todos y cada uno de nosotros podamos tener

la mejor ley municipal esas son las razones por lo tanto del voto favorable del grupo

el grupo socialista trae a la cámara esta proposición de ley

que trata de ser el primer paso para la aprobación de una ley que los socialistas consideramos absolutamente necesaria especialmente porque ha sido tantas veces postergada

y más urgente aún cada día que pasa basta oír la voz de los ayuntamientos y de sus representantes sean del color ideológico que sean para percatarnos de esa realidad y lo que nos están diciendo los ayuntamientos es algo muy claro nos están diciendo que los ayuntamientos vascos

el treinta por ciento de sus gastos aproximadamente quinientos cincuenta y dos millónes de euros a servicios que no les competen que la situación financiera de los ayuntamientos

de demanda de servicios sociales a la que no se puede prestar la atención debida y nos dicen también de manera reiterada que es necesario por eso mismo concretar de una vez

garantizar la financiación suficiente para poder asumirlas y garantizar igualmente que los ayuntamientos estén representados para ello con voz y con voto en el consejo vasco de finanzas públicas y todo eso se resume en una reivindicación unánime

que acabe con la actual inseguridad jurídica de los ayuntamientos y les dote de competencias y de recursos suficientes para atender las demandas de los ciudadanos una reivindicación que no es del partido socialista una reivindicación planteada con insistencia en los últimos años tanto por el anterior presidente de eudel jokin bildarratz como por la actual presidenta

cuando compareció ante la comisión de duplicidades de este mismo parlamento una reivindicación que el gobierno anterior hizo una prioridad de su mandato y en coherencia

en mitad de la legislatura y lo hizo después de un proceso de diálogo muy intenso y muy productivo por cierto con los más interesados en que la ley saliera adelante con la asociación de eudel que agrupa a los ayuntamientos

importantísimas líneas de consenso después de más de treinta años de autogobierno lo que no pudieron o no quisieron hacer gobiernos con lehendakari nacionalista

lo hizo un gobierno que apostó desde el primer día por la recuperación del estatuto y su desarrollo y un gobierno además de probada sensibilidad municipalista

y por eso se tomó todo el tiempo necesario y fue mucho para que el proyecto de ley que se remitiera a la cámara contara con las aportaciones de los entes municipales como así fue después de más de treinta años de autogobierno sin ley municipal llegaba a este parlamento en tiempo y forma un proyecto de ley municipal de la mano de un gobierno que apostó por el desarrollo de las competencias de los ayuntamientos como todo ustedes saben casi desde el principio la tramitación de este proyecto

y deliberadamente retrasada porque fue impugnado por el partido nacionalista vasco y por el partido popular ante la comisión arbitral por supuesta invasión de competencia

y conocen también perfectamente lo que la comisión arbitral dijo que no existía tal invasión de competencias para tranquilidad plena de los ayuntamientos por si hubiera dudas de legalidad que el texto del gobierno de patxi lópez garantizaba

que el único obstáculo que puede haber para que tengamos ley municipal en euskadi para que los ayuntamientos puedan prestar los servicios que le reclaman sus ciudadanos no es otro que las lecturas restrictivas del foralismo que hicieron las diputaciones de bizkaia y de álava que son las que recurrieron el proyecto

además de forma bastante evidente de que la ley no saliera adelante en la pasada legislatura el texto presentado por el grupo socialista que recoge

que impulsó el anterior gobierno sigue siendo a día de hoy la única propuesta seria y concreta que existe para la elaboración de una ley

esta es la única propuesta que ha sido trabajada a fondo además con los agentes políticos e institucionales la única propuesta que viene avalada por el mayor consenso alcanzado hasta la fecha con los ayuntamientos vascos la única propuesta que cuenta con garantías jurídicas suficientes como las establecidas por la comisión arbitral y además no existe alternativa conocida a la proposición que planteamos la que se conoce hasta la fecha

no es otra que volver a dilatar en el tiempo la ley municipal a juzgar por los argumentos en que basa su criterio desfavorable a esta iniciativa porque el gobierno de urkullu lo que nos da a entender en su escrito desfavorable a la toma en consideración

como si no hubiera ya un trabajo serio avanzado de más de año y medio avanzado por el anterior gobierno nos dice que volvemos a tener que empezar a tejer contactos

y nos dicen además algo mucho más sorprendente todavía y es que las instituciones vascas parece ser que tenemos que esperar

para que los representantes políticos de los ciudadanos vascos podamos aprobar en el uso de nuestras competencias el marco legal

porque eso es lo que viene a decir cuando el gobierno afirma que tenemos que estar a resultas de lo que ocurra con ese anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local

porque la ley municipal regula algo muy concreto las competencias municipales que nos corresponden en virtud del estatuto de autonomía de gernika

que es lo que se pretende aprobar por el gobierno de españa deberán regular todo aquello que sea de competencia estatal y no de competencia exclusiva del país vasco y resulta bastante sorprendente la verdad que a un gobierno vasco de verdad un gobierno vasco vasco como ha dicho en alguna ocasión el lehendakari urkullu muestre tal grado de sumisión al gobierno de españa

de nuestra política turística nos diga ahora que hay que esperar a que el gobierno de españa decida previamente sobre algo que nosotros tenemos que decidir salvo que esto sea un anticipo de esa especie de nuevo status político que nos anuncia el lehendakari urkullu o un ejemplo más del ritmo

a esta emergencia nacional que tiene el país pero aquí tenemos una verdadera emergencia una emergencia municipal y desde hace muchos años que la tienen los ayuntamientos

de sus ingresos y ahí está el caso más dramático de la treintena de ayuntamientos vizcaínos que se han visto obligados a solicitar la ayuda de la diputación con ampliaciones de créditos para hacer frente a sus deudas alrededor de treinta millónes de euros

de aplazamiento de la reintegración a la diputación de las liquidaciones anuales correspondientes de lo recibido por el fondo foral de financiación municipal porque no les llega el dinero y porque está habiendo casos de ayuntamiento que tiene que recurrir a operaciones de rescate

desde el ayuntamiento de bilbao de recortar servicios en competencias que hasta ahora se venían ejerciendo por el ayuntamiento pero que no le son propias o al menos no le son exclusivas por no hablar de que cuanto más tardemos en tener una ley municipal más se va a cuestionar como ya se está haciendo un organismo como eudel interlocutor necesario

son todos estos datos que nos hablan de la necesidad de abordar de verdad y con urgencia un problema aún sin resolver un problema que tiene que ver con el cierre definitivo de la institucionalización de este país y tiene que ver sobre todo con la eficacia y la profundización de las políticas de bienestar

como entes representativos más cercanos porque hablar de esta ley de la ley municipal y hablar de competencias y recursos de los ayuntamientos es hablar también de ayudas sociales

de urbanismo de políticas de vivienda de juventud de empleo y de tantas y tantas cuestiones que tienen que ver directamente con la vida diaria

asumiendo muchas veces competencias que no les son propias y en muchas ocasiones con una notable carencia de medios por eso los socialistas vascos estamos convencidos

como agentes institucionales que trabajan por un futuro de progreso para este país como instituciones con voz propia que trabajan en pie de igualdad

y con proyectos y recursos compartidos para sacar el país adelante como instituciones imprescindibles en el desarrollo de las políticas sociales y así lo reconocen además las leyes otra cosa es que al final no se puedan cumplir porque no se tienen medios para hacerlo

y como instituciones claves en materia de creación de empleo también en eso y esta no es una afirmación retórica nos la creemos de verdad

tuvo con los ayuntamientos para la creación de puestos de trabajo en las zonas más deprimidas de este país como quiero recordar el pleno engarce

compromiso municipalista con la primera decisión de calado social que tomó el gobierno anterior el aumento de más de veinte millónes de euros para ayudas de emergencia social

fuera del signo político que fuera y no sé a este gobierno

la ley municipal le corre prisa y a los alcaldes

y a este parlamento que la pasada semana decidió por amplia mayoría que la aprobación municipal de la ley municipal debiera ser una prioridad de la presente legislatura eso recogía también el texto de aquella enmienda transaccional y es además un momento especialmente oportuno para trabajar en esta ley

bastante más amplia la enmarcada en los trabajos de la ponencia parlamentaria que hemos aprobado para revisar nuestro entramado institucional y hacerlo así más útil para los ciudadanos vascos

con qué competencias y sobre todo con qué financiación podemos llegar a hacer lo propio con el resto del entramado institucional vasco en un debate que queremos que sea integral y no parcial y que vayamos acompasando en función de las circunstancias hoy

la votación de hoy no tiene como objetivo decir si nos gusta o no nos gusta esta ley si coincidimos con todos sus planteamientos o dejamos de hacerlo

de dar el visto bueno simplemente a la toma en consideración de esta proposición de ley y yo entiendo que haya diferencias entre los diferentes grupos sobre su valoración

pero se trata hoy de decir si este parlamento en un ejercicio de responsabilidad y de compromiso democrático con los ayuntamientos da el visto bueno para que siga adelante

de presentar enmiendas sugerencias o modificaciones por eso nos parece importante que tenemos que hacer posible que esta ley salga adelante como un gran objetivo de país

para adelantar este trabajo que nos parece que lleva ya más de treinta años de retraso por eso y por no otra cosa hemos presentado esta proposición de ley que esperamos de verdad sinceramente que sea tomada en consideración por este parlamento

que ya hemos debatido en las numerosas modalidades que nos permite el reglamento de esta cámara a través de proposiciones no de ley

etcétera etcétera y volvemos a debatir sobre la ley municipal convendría comenzar aceptando convendría compartir algo

reconociendo algo políticamente doloroso en cualquier caso y que esta es la historia de un fracaso es la historia de un fracaso de esta cámara y es la historia de un fracaso de la política vasca la ley municipal

vasca y de esta cámara y convendría que empezáramos reconociendo las verdades porque la política vasca también

está en demasiadas ocasiones protagonizada y abandera por la reivindicación permanente por las propuestas de reformas estatutarias

reivindicaciones también y propuestas de nuevos estatutos de nuevos marcos jurídicos para euskadi es decir la política vasca en demasiadas ocasiones está abanderada por la queja y por el lloro y

tanto es así que quienes más tiempo han tenido responsabilidades de gobierno en euskadi que son ustedes

en diversos grados institucionales en diversas responsabilidades instituciones y también en

y quienes más intentos han hecho por materializar esa queja a través de

y de rupturas de marcos de convivencia en cualquier caso de nuestro estatuto de autonomía

aunque es también cierto y asumámoslo que después de treinta y cuatro años de estatuto de autonomía

representadas en este parlamento es decir todos somos en parte responsables también hay que asumirlo y reconocerlo responsables de no tener una ley municipal vasca no es menos cierto que quien más responsabilidad de gobierno ha tenido quien más peso político ha tenido en la gestión de los intereses de euskadi algo más de responsabilidad podemos aceptar también en un ejercicio de sinceridad algo más de responsabilidad puede tener el que no tengamos hoy aun una ley

en euskadi cabe preguntarse también porque es lógico y me parece un ejercicio también necesario

si en lugar de tantas propuestas rupturistas de tantas propuestas maximalistas abocadas al fracaso desde un inicio y todos los sabíamos

de una perdida de tiempo precioso cabe preguntarse qué hubiera sucedido si quienes tanto tiempo han gobernado en euskadi si ustedes si el partido nacionalista vasco

qué habría pasado en euskadi dónde estaríamos hoy cuál sería nuestro músculo real competencial y desde luego hay una respuesta también que

pero bien más allá de estas consideraciones y más allá de esta reflexión en voz alta lo que el grupo parlamentario popular tiene claro

podemos volver a fracasar no podemos volver a fracasar no nos podemos ya permitir este lujo porque sería de vergüenza ajena y propia y desde luego no podemos volver a fracasar entre otras cosas por incomparecencia o por búsquedas de fotos

si esta va a ser la legislatura del rigor y esperamos que sí señor lehendakari si esta va a ser la legislatura de la gestión y esperamos que sí señor lehendakari y si esta va a ser la legislatura del trabajo y la dedicación a las cosas que de verdad importan estamos absolutamente convencidos que tendremos ley municipal y tendremos

de nuestra capacidad y en nuestro ámbito competencial que nos darán lo que les decía músculo

que tenemos ya pero desde luego que nos vienen a futuro pero no así no de esta manera creemos que esta manera es equivocada señor pastor

y sobre todo con la experiencia que tenemos de los fracasos anteriores y sabemos también por qué se ha fracasado no vamos a poner paños calientes

para haber desarrollado una ley municipal las que he numerado al principio porque no

de consideraciones lo primero que tenemos que hacer es no funcionar a golpe de proposición de ley

porque no podemos funcionar a golpe de búsqueda de foto no debemos de funcionar en una materia tan sensible y tan importante de tanta trascendencia no debemos de funcionar a búsqueda de titular de prensa

lo que hay que hacer es trabajar con rigor con lealtad institucional por supuesto y dejando probablemente de lado algunos intereses particulares

con las diputaciones es una obviedad y hay que contar también con el resto de las formaciones políticas representadas en este parlamento yo creo que también parece una obviedad

de lo que está pasando en el mundo y de lo que está pasando en el mundo más cercano de lo que está pasando en el conjunto de españa y hay que coordinarse claro que sí claro que sí hay que coordinarse con la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que como es obvio

competencial y de gestión en nuestra comunidad autónoma porque es una ley y es verdad que tenemos

perfectamente establecidas pero es una ley que sí va a afectar señor pastor porque va actualizar y va a clarificar competencias municipales

pretende eliminar también duplicidades de gestión porque va a hablar de garantías de cobertura financiera otro de los grandes déficit que

del sector público local y porque va a fortalecer figuras que también influyen en el desarrollo de nuestros ayuntamientos

con habilitación nacional interventores etcétera etcétera es decir es una obviedad que va a influir y es por lo tanto una obviedad también

de una vez por todas tener en cuenta por lo tanto parece lógico sensato y razonable que la ley municipal vasca nazca desde la seriedad y del trabajo compartido trabajo compartido y también

que nazca desde la coordinación institucional y como les decía antes no a través de proposiciones de ley

muy graciosa en relación con creo que hablaba de

que para meter el dedo en el ojo al pnv ha estado muy bien y seguro

en cierta manera pero claro aquí yo no creo que estamos para ver quién tiene más bemoles o para ver quién pone sobre encima de la mesa no sé qué cosas estamos para hacer el trabajo bien y yo creo que ese tipo de actitudes

en este caso que se está legislando o qué se va a legislar en el congreso de los diputados

la legislación autonómica con aquellas cuestiones que le van a afectar porque luego los problemas serían mayores yo creo que esa forma de entender la política de meter el dedo en el ojo al contrincante insisto

pero es poco práctica y si queremos desatascar un debate objetivamente atascado como es la ley municipal no parece muy buena carta de presentación andar metiendo el dedo en el ojo a no sé quién porque

el efecto contrario por lo tanto coordinación responsabilidad trabajo y mucha mucha seriedad y solo así conseguiremos que lo que ha sido una historia de fracaso entorno a la ley municipal se cambie y se convierta en una historia de éxito que desde luego los ciudadanos y nuestros ayuntamientos

dagokionez jakinda gainera uste dot ahaztu jatzula que la ley de bases de régimen local zuen

udal legea onartzea lehentasuna dela guztiontzat y es que todos los grupos estamos de acuerdo en la necesidad de contar de una vez por todas con nuestra propia

tiene que ser fruto de un consenso político previo

aquellas instituciones afectadas directamente por la ley y es intención de este gobierno iniciar las negociaciones en el más breve posible para conseguir el consenso político del que tiene que partir la ley ese es el objetivo y ese es el compromiso del gobierno del lehendakari

del consenso no solo entre partidos políticos también entre las instituciones implicadas pero parece ser

el partido socialista y ahora parece ser que les han entrado las prisas

con su proposición de ley municipal nos presentan esta iniciativa sin ni tan siquiera haber dado la oportunidad al gobierno de presentar su calendario

se le nota a usted señor pastor un poquito inquieto y es que el propio lehendakari le ha contestado que todavía no han transcurrido ni dos meses

su gobierno tardó siete meses en presentar el calendario legislativo y además fíjese

postura totalmente antagónica a la suya porque

desde el consenso político previo como lo vengo indicando una y otra vez y fíjese el señor salinero el secretario general de presidencia reconoció

cuando vino a informar sobre el proyecto de ley municipal que traía la ley al parlamento sin un consenso político previo es más reconoció que únicamente había hablado con el partido popular

separado matrimonio psoe pp se tiraban los trastos a la cabeza literalmente dicho en las palabras del señor salinero además

que existe una evidente contradicción con la enmienda que firmaron con la postura que mantienen hoy y con la enmienda que firmaron la semana pasada

notar también el señor damborenea es evidente la contradicción que existe entre ir presentando enmiendas a una proposición de ley

cuando por otra parte hemos creado una ponencia para analizar precisamente todas estas cuestiones pero en fin pues cada uno lleva como puede sus propias contradicciones decía que

las prisas presentan esta iniciativa sin dar la oportunidad al gobierno a traer aquí su propio calendario legislativo pero las prisas como digo les entran ahora porque cuando estaban ustedes en el gobierno

para traer este proyecto a la cámara este proyecto

sufrió además retrasos en su calendario y además a pesar de lo que diga el señor pastor trajeron el proyecto a la cámara sin aportar todos los informes y documentos requeridos de que no acompañaron el preceptivo informe de la oce en definitiva reitero

va a trabajar por conseguir un consenso político previo para elaborar esta ley consenso y diálogo también con el resto de las

acompasando estos trabajos a las conclusiones que se vayan obteniendo de la ponencia encargada de revisar nuestro sistema institucional besterik ez

acababa diciendo la representante del pnv cada uno lleva sus contradicciones como puede supongo que lo dice por experiencia propia porque claro ir por la vida de partido municipalista y llevar treinta y cuatro años de retraso no queriendo traer nunca a este parlamento la ley municipal

que llevamos muchos años oyendo al inicio de cada legislatura de gobiernos nacionalistas que la ley municipal era una prioridad en todas ellas y en todas ellas cuándo entraba la ley

que como el gobierno socialista sí se preocupó de verdad de trabajar la ley municipal y la quería traer cuanto antes a esta cámara

con eudel y el ochenta por ciento de las aportaciones de eudel están recogidas en este texto y por lo tanto el problema es que cuando uno lee el criterio del gobierno sobre la toma en consideración a mí sinceramente se me ponen los ojos como platos porque la argumentación que ha dado usted aquí no no es que un proyecto de ley

tiene que haber no sé cuantos informes del gobierno claro pero es que este proyecto de ley los tenía y los tiene de cuando los presentó el gobierno o es que ustedes parece que vienen aquí como si fueran adanistas han llegado ustedes aquí y han descubierto euskadi

en concreto el anterior que es gobierno también aunque no sea del pnv que hizo su trabajo y por cierto lo hizo bien y si como usted dice llegó tan tarde al parlamento vasco en el dos mil once es porque ustedes se preocuparon de retrasarlo todo lo posible

claro cuando las diputaciones se enquistan y paralizan y bloquean y recurren por sistema para que eso no se dé pues es lógico que se retrase lo que ya es el esperpento es que encima nos acusen ustedes a nosotros de haber provocado ese retraso si fue intencionado si ustedes lo que no querían y lo que no quieren porque le tienen miedo

porque abre un melón que ustedes no están dispuestos a asumir y después

que rechace el argumento de que tenemos que esperar a la ley estatal es que no es verdad la ley estatal como legislación básica

pero nosotros aquí en euskadi tenemos competencias exclusivas reconocidas en el propio estatuto con carácter perfectamente establecido

que nos da capacidad para establecer ese marco normativo todo esto es disimulo todo esto es artificio todo esto es justificación de lo injustificable porque ustedes como no consideran válido

pues parece que las leyes o los proyectos de ley que emanen de aquel tampoco entonces porque vienen a decir que este proyecto de ley de dónde ha salido si sabe usted perfectamente

por lo tanto con todos los trámites legales pertinentes no se puede decir

y ahora hay otro gobierno pero aquel también era gobierno y por lo tanto con los trámites cumplidos perfectamente

la confianza que usted demuestra ahora en la voluntad del pnv demostrada en treinta y cinco años de traer cuanto antes la ley municipal a este parlamento en fin yo

parece que no estamos en el momento porque han pasado muchos años décadas

una y otra vez su compromiso de traer la ley municipal y en fin me ha dado la impresión de que usted navegaba disimulaba un poco

con argumentos como los del consenso lo de trabajarlo pero si sabe usted que estuvimos año y medio

tiene todos los consensos previos y además hoy ni siquiera estamos discutiendo el texto de la proposición de ley estamos discutiendo solo si le damos

lo que dice de las diputaciones o le gusta poco que el problema es ese su concepto foralista del país

tiene la suficiente calidad democrática como para permitir que un proyecto de ley se pueda discutir y en la discusión cada uno presentará lo que estime conveniente pero ustedes niegan siquiera la discusión ese es el problema de fondo en todo caso el debate hoy ha sido muy clarificador verdad

en la defensa de los ayuntamientos pero ustedes y parece que los señores de bildu también tendrán que explicar a sus alcaldes por qué hacen hoy lo que hacen

su propia ley y lo hemos visto hasta hoy en el pnv y en el partido popular pero ahora parece ser a la luz de lo que conocemos que el frente foral se ha ampliado con la incorporación de euskal herria bildu forma parte

abstenerse o votar en contra de este proyecto de ley de aquellos que han hecho de las competencias y de la autonomía municipal llevada al paroxismo parte de su eje de discusión ahora parece que se alinean con las tesis del partido nacionalista vasco y del partido popular es decir

ha acabado absorbiendo también la reivindicación del papel político de los ayuntamientos que hasta ahora parece que euskal herria bildu defendía o exhibía hasta la fecha

todos los ayuntamientos regidos también por ustedes ya saben lo que pueden esperar de la política de euskal herria bildu y saben también que si tienen que criticar las actitudes obstruccionistas de los entes forales no se le puede achacar solamente a la diputación de bizkaia y álava también a ustedes porque le recuerdo varios meses sin nombrar representante de la diputación foral de gipuzkoa a la comisión arbitral donde se dirimía este proyecto

que voto evidentemente en contra del dictamen de la ley municipal que a pesar de todo avaló la comisión arbitral por lo tanto

la casulla foral imprime carácter y pesa mucho más que los ayuntamientos y sus intereses

de sus actos pero sinceramente créanme ustedes que nuestros alcaldes los suyos y los de todos no van a entender nunca

volvamos otra vez a frustrar las aspiraciones de autonomía municipal de todos los ayuntamientos vascos eskerrik asko pastor jauna

claro estos relatos de un mundo de buenos y malos estos relatos de trazo grueso en el que unos son municipalistas y los otros quieren ahogar a los ayuntamientos

y uno además lógicamente se pone en el lugar de los buenos por supuesto cuando lo cuenta tienen

pero yo creo que en esta cámara y sobre todo hablando de temas tan importantes

si efectivamente son treinta y tantos años treinta y cuatro treinta y cinco de fracasos

de que pocas leyes nos quedan tan importantes por desarrollar por legislar como la ley municipal de tanta trascendencia y además de tanta trascendencia no solo política sino de trascendencia en la vida real de los ciudadanos

quizás de una manera excesivamente pedagógica es que funcionar a golpe de proposición no de ley sin hablar con el resto de los grupos políticos

sin ni tan siquiera haber tenido la oportunidad de haber chequeado otra vez con los municipios con las diputaciones con nuestras ciudades es decir con los directamente afectados nos parecía en cualquier caso una frivolidad y nos parecía un intento de buscar un titular y una foto

para hablar de buenos y de malos de municipalistas y de en cambio los que no queremos el desarrollo de los ayuntamientos

explicarle y lo que intentaba es explicarle además también que si se está legislando

en cortes generales la tramitación de una ley que va a afectar objetivamente no sabemos en qué grado pero va a afectar objetivamente

a los ayuntamientos en sus niveles competenciales pues que también parece razonable que esperemos un poquito y que el gobierno presente

de los ayuntamientos y de las diputaciones y vuelvo a decirle algo que usted no ha dicho en su intervención es una solución yo creo que es importante también que asumamos también cada uno una cuota de responsabilidad por los fracasos los políticos nos arrogamos muy fácilmente los éxitos

porque nadie nos las pone fuera pero poca credibilidad transmitimos a los ciudadanos y en un momento como el actual estamos muy necesitados de credibilidad si no hacemos algo de autocrítica también sobre nuestros propios pasos nuestros propios hechos ustedes han gobernando es cierto han tenido la lehendakaritza una legislatura

y no ha habido ley municipal y seguro que la responsabilidad es en buena medida compartida seguro

por parte de otras instituciones pero oiga es que ustedes gobernaban

el cero se lo tiene que arrogar en primer lugar quien ha gobernado no lo ha recordado pero es que ustedes también han tenido responsabilidades de gobierno en el pasado ustedes han gobernado con el partido nacionalista vasco y en esos años de gobierno

y cero sobre eso también entonces señor pastor ni buenos ni malos ni yo estoy libre de todo y los demás son los culpables empecemos reconociendo la realidad que es un buen paso

hablemos mucho más busquemos menos fotos y busquemos los consensos en una ley fundamental

no por mucho madrugar amanece más temprano o que las prisas

egun on guztioi egun on lehendakari jauna a mí me parece muy bien que la izquierda radical

haya descubierto las instituciones en esta nueva fase les estábamos esperando durante mucho tiempo y bienvenidos pero habrá que respetar los tiempos y las formas

en esta nueva fase les estábamos esperando durante mucho tiempo y bienvenidos pero habrá que respetar los tiempos y las formas ongi etorria zuei

persigue un objetivo concreto dejar sin efecto los recortes que hemos mencionados que he mencionado anteriormente que este colectivo recupere

las cantidades que se le adeudan como consecuencia del recorte impuesto en el año dos mil doce

gobierno adquiera el compromiso de no recortar las ayudas sociales en los presupuestos dos mil trece bere momentuan

se dice que lo que perdemos en un año se tarda veinte

nosotros proponemos que lo que se ha perdido en un año se recupere en un solo año

aburtok esandakoa es necesario tejer una especie de red que proteja a los ciudadanos y a las ciudadanas que atraviesan

adierazitakoa debemos proteger y mejorar el bienestar social de las personas ordua da diskurtsoetatik haratago

presentadas por el grupo nacionalistas vascos

a favor de tomar medidas que favorezcan a las personas que se encuentran sin empleo sin ingresos y que son en este momento totalmente vulnerables en nuestra sociedad bereziki harritu nau eusko alderdi jeltzaleak

tomas las medidas necesarias aztertu eta horrelako

después de lo que estamos oyendo hoy mismo

para venir aquí hablando de fraude y control en las ayudas sociales

justo del empleo y de la riqueza la situación sería otra beraz inoiz baino gehiago beharrezkoagoa da

buenos días señorías intervengo en este parlamento en representación del grupo socialistas vascos con el fin de debatir la proposición no de ley presentada por el grupo eh bildu relativa a la delegación de las políticas presupuestarias realizadas en las ayudas sociales para el anterior gobierno vasco

y que como todos sabemos tenían un carácter temporal limitado al año dos mil doce así como defender la enmienda transaccional acordada entre mi grupo parlamentario y el grupo nacionalistas vascos consideramos que el parlamento vasco se debe ratificar en la conveniencia

dentro de una estrategia integral de inclusión activa uniendo a las medidas relativas a las garantías de ingresos y a la inclusión social las medidas orientadas a la inclusión laboral efectiva quisiera señalar que el objetivo fundamental de la reforma

dieciocho barra dos mil ocho como la reforma de la misma recogida también en la ley cuatro barra dos mil once es la activación para el empleo era pasar de un modelo asistencial a un modelo de activación dado que ya no hay un modelo asistencial en ningún país europeo pero antes de entrar en el fondo quisiera indicar que no procede lo planteado por el grupo parlamentario eh bildu

que considera que de acertarse dicha derogación entraría de nuevo en vigor la anterior redacción existente antes de la reforma

las leyes solo se pueden derogar por otras posteriores y además

derogación de una ley no recobran vigencia las que esta hubiera derogado

el texto anterior a la modificación del indicado artículo voy a entrar en el fondo la ley indicada constituyó una reforma del modelo de gestión y de filosofía

a lanbide servicio vasco para el empleo evitando así que esta prestación pase por tres administraciones para ser gestionada estableciéndose un sistema más eficaz y además en vez de gestionarse por los servicios sociales pasaba a ser gestionado por los servicios de empleo

el derecho de disponer de recursos económicos para atender las necesidades básicas y también el derecho a recibir apoyos personalizados para facilitar su inserción social y laboral

deben ir acompañados de obligaciones y la responsabilidad de un gobierno es establecer un sistema de protección social que sea solidario y sostenible sería bueno recordar que los requisitos de acceso recogidos en la reforma

con esta reforma hicimos un acto de responsabilidad con ello no solamente apostamos por un cambio de modelo por un cambio de modelo asistencial a un modelo de activación para el empleo

que sobre algunos derechos que hay que sostener solidariamente con el esfuerzo de toda la ciudadanía hay que establecer también algunos requisitos

regulaba una reducción temporal del siete por ciento para prestaciones de garantías de ingresos y para la inclusión social así como

para el indicado periodo estableciendo una cuantía máxima para la misma de doscientos cincuenta euros mensuales dicha reducción tenía una razón de ser en la necesidad

dos mil doce repito durante el dos mil doce dado la reducción de ingresos en el ejercicio anterior sin que se esperara un cambio de tendencia de dicha situación para el año pasado

nos costó mucho plantear algunas de las modificaciones introducidas en dicha ley sí pero fue necesario dado que el volumen de ingresos se había reducido a lo largo de los últimos tiempos pero sobre todo al no haber podido acometer como los socialistas propusimos durantes los últimos cuatro años la reforma fiscal que se precisaba lo que impidió que contáramos con recursos suficientes ilustraré esta afirmación con datos

en el dos mil nueve de tres mil setecientos cuarenta y ocho en el dos mil diez de seiscientos dieciocho

que el total del desfase de recaudación en el año dos mil ocho y dos mil nueve

y los años dos mil diez dos mil once y dos mil doce el desfase fue de tres mil novecientos trece el gobierno socialista en su trayectoria ha duplicado durante este periodo lo invertido en ayudas sociales respecto de lo invertido por el gobierno anterior es decir que se ha efectuado en la última legislatura un esfuerzo en seguir manteniendo las ayudas sociales

recaudatorio sufrido en unas cifras que no se hicieron ni en época de bonanza económica

una posición política forzada por una coyuntura económica para el año dos mil doce

en este nuevo debate los que no querían una reforma fiscal antes ahora sí la quieren y hablan de más ingresos los que fijaron una recaudación a la baja

como no podría ser de otra forma si cambian las expectativas de ingresos también pueden cambiar las políticas que tienen una duración limitada si hubiéramos podido cometer entonces y a tiempo dicha reforma fiscal

pero no conseguimos apoyos de otros grupos para acometerla en ese momento con este proyecto se garantizaba el derecho a percibir una prestación a través de renta de garantía de ingresos a quienes lo necesiten porque se garantiza que quien deje de percibir la prestación por desempleo

podrá completarla y se mantiene el derecho a la prestación complementaria de vivienda en tercer lugar en la enmienda de transacción

lo abonado en el año dos mil trece por lo que rechazamos la creación del fondo especial para compensar los recortes realizados en el ejercicio anterior por otra parte además hay que

sino se dispusiera lo contrario es decir que no se puede dar efectos retroactivos para crear ese fondo

en cuarto lugar creo importante por otro lado que el parlamento inste al gobierno vasco a garantizar las ayudas sociales en los presupuestos del dos mil trece teniendo en cuenta la especial vulnerabilidad

en virtud del cual la persona titular de la rgi como los miembros de las unidades de convivencia que se encuentren en edad laboral

cuando de forma extraordinaria sea requerido por la administración a través de las organizaciones de acción voluntaria del territorio con las salvedades obviamente previstas en el indicado artículo no voy a entrar aquí en la cuestión de si sería conveniente o no

como ha planteado el grupo parlamentario de los populares vascos porque

y va más allá de lo indicado en la ley cuatro barra dos mil once solo adelantaré que los socialistas vascos defendemos la corresponsabilidad pero también defendemos los derechos laborales y debemos ajustar muy bien los dos principios por tanto termino defendiendo lo recogido en la enmienda de transacción la necesidad de que el parlamento vasco

y a que tome todas las medidas necesarias a fin de seguir trabajando

también vuelvo a resaltar la necesidad de revisar la situación en la medida que de producirse una modificación de ingresos de acometerse una reforma fiscal se cambien también las políticas que pudieran seguirse

pero para poder tener una idea clara de en qué cifras nos movemos es conveniente también que el parlamento vasco inste al gobierno vasco a que dé cumplida cuenta a la finalización de cada periodo de sesiones

en lambide para un mejor control y por último la conveniencia de que el parlamento vasco inste al gobierno vasco a garantizar las ayudas sociales en los presupuestos del dos mil trece a la especial vulnerabilidad de sus perceptores señorías

a partir de los nuevos datos que se están barajando en estos momentos dado que se está debatiendo solo

participará en un debate a fondo aportando ideas sobre cómo se tienen que seguir aplicando las políticas sociales dentro de un sistema vasco de garantías de ingresos e inclusión social

ningún problema porque como confiamos en el estado de derecho en sus mecanismos y en la justicia sabemos que aquellos que delinquen

con estos temas no tiene como se puede comprender ningún problema

cuando son ustedes los que avalan a aquellos que no defienden el derecho fundamental de las personas que es el derecho a la vida bestalde

aumenta y está aumentando significativamente el número de perceptores de ayudas sociales y en consecuencia también el esfuerzo presupuestario que tienen que hacer las diferentes administraciones públicas

para hacer como digo frente a estas necesidades casi la mitad del presupuesto

del sistema de garantía de ingresos el sistema de protección en euskadi es uno de los más avanzados de toda españa

es uno de los sistemas más solidarios con las personas en situación de necesidad y con un desembolso como decía económico mucho mayor que en otras comunidades autónomas

de las personas que perciben ayudas sociales la transferencia de las políticas activas de empleo y la creación de lanbide servicio vasco de empleo

renta de garantía de ingresos y prestación complementaria de vivienda abría y abrió una oportunidad para conectar la percepción de una ayuda social con la búsqueda

son empleables también los datos nos dicen y sabemos que el cuarenta y cuatro por ciento de los perceptores llegan a rechazar un empleo el gran reto por tanto es la inclusión laboral es el empleo en definitiva

de salida con el acuerdo alcanzado la pasada legislatura se introdujeron los siguientes aspectos muchos hay que decirlos a instancia del partido popular se introdujeron muchos aspectos en la normativa vigente por un lado la revisión de los requisitos de acceso así como la revisión del cumplimiento de los requisitos a lo largo de la percepción de las ayudas se estableció el requisito de tres años de empadronamiento

por otro lado se han incluido nuevas obligaciones entre los perceptores de ayudas sociales entre las que destaca la obligatoriedad de mantenerse tanto la persona titular como los miembros de su unidad de convivencia que se encuentran en edad laboral disponibles para la realización de trabajos extraordinarios en beneficio de la comunidad cuando

a través de organizaciones de acción voluntaria obviamente quedan exceptuados las personas titulares de pensiones de invalidez

de tal cometido por diversas circunstancias también el derecho a la renta de garantía de ingresos se extingue si se rechaza un empleo anteriormente se permitía hasta tres veces rechazar un empleo para que se extinguiera tal derecho

eso sí cuando era consejera porque todos sabemos que antes de ostentar responsabilidades de gobierno mantenía otro discurso

lo siguiente la transformación de una política de protección social basada en el empleo y no en el subsidio es el reto más apasionante que se puede afrontar

es la activación para el empleo de quienes alejados de él solo tienen un futuro de cronificación

esto decía la señora zabaleta la pasada legislatura no así en anteriores legislaturas pero como decía coincidimos con estas afirmaciones

y evitar situaciones de fraude que las hay y es algo que no podemos obviar en este sentido

lo volvimos a solicitar la pasada legislatura y fue posible llegar a un acuerdo en este punto con el partido socialista

aprobado en dos ocasiones en esta cámara el tres de febrero de dos mil once y el quince de marzo de dos mil doce se plasmó en dos textos aprobados que señalaban lo siguiente

los mecanismos de inspección control y seguimiento para evitar el fraude en las prestaciones previstas por lo tanto como decía es un acuerdo que está aprobado con una mayoría con los votos del partido popular partido socialista partido socialista partido popular la pasada legislatura por ello actuando con absoluta coherencia como siempre lo hemos hecho en la enmienda que hemos presentado de uno esos los puntos nos referimos al acuerdo antes señalado puesta en marcha de los mecanismos

a los que acabo de referirme lamento que el partido socialista que lo suscribió la pasada legislatura

cada cual tendrá que explicar sus cambios de posición sus idas y venidas en un tema bastante delicado cada uno como se decía aquí esta mañana también tendrá que explicar sus propias contradicciones

esencial por una cuestión de mera coherencia política es importante que habiéndose detectado deficiencias en el funcionamiento de lanbide se arbitren las medidas necesarias para mejorar su funcionamiento y que

la situación de lanbide como estamos constatando exige actuaciones concretas y sin demora esta semana hemos conocido el dato de que en los últimos dos años se han producido un incremento del cincuenta por ciento de las reclamaciones ciudadanas realizadas frente al ararteko por la subida de las reclamaciones relacionadas con las ayudas sociales

derechos sociales aparte desde su puesta en funcionamiento hemos conocido que ha habido retrasos en la tramitación de las ayudas saturación del servicio en determinados momentos en definitiva cierto caos que exige medidas concretas

esas deficiencias que está teniendo lanbide en su funcionamiento finalmente

presente en esta cámara un informe semestral sobre los expedientes tramitados y en tramitación

así como todas las actuaciones realizadas en relación al cumplimiento de los fines del servicio vasco de empleo sí que es cierto que esta cuestión

se nos ha presentado una enmienda de transacción suscrita por estos dos grupos que tengo que decir que a pesar de que incorpora algunas de las cuestiones contempladas en nuestra enmienda como la que acabo de referime no lo hace con toda la claridad y además se ha obviado el acuerdo tomado en esta cámara sobre la puesta

control y seguimiento que para nosotros como pueden imaginarse es una cuestión absolutamente crucial una cuestión crucial no solo porque lo quiera el partido popular

a las personas que realmente lo necesitan

con un incremento de los perceptores y de las situaciones de necesidad si deseamos la continuidad de un sistema de protección de los más avanzados no solo de españa si no de europa

de las administraciones públicas y en concreto por la administración pública competente que en este caso es el gobierno vasco al tener lanbide la competencia de la gestión tramitación de las prestaciones económicas como son la rgi o prestación complementaria de vivienda

situaciones abusivas que todos sabemos que existen y ante las cuales no podemos mirar para otro lado

que acabamos de comenzar y que acaba de comenzar apoyaremos nuestra enmienda y tengo que decir que aunque la enmienda del partido nacionalista vasco

propuestas no recoge una cuestión fundamental que es el tema de los mecanismos de control inspección y seguimiento

transcurrido un año escaso de su aprobación eh bildu pretende volver atrás pide la derogación de varios artículos de la ley cuatro barra dos mil once en concreto

de la comunidad autónoma en primer lugar hemos de decir que la derogación de los artículos de la ley cuatro barra dos mil once que menciona bildu no supone la entrada en vigor de los artículos derogados ya se lo han dicho también aurreko

necesaria una nueva tramitación legislativa tendrían que regularse de nuevo

y volver a lo establecido en la ley de dos mil ocho o a lo que se estime oportuno de hecho

votó en contra de la ley de dos mil ocho porque no le parecía suficiente la protección regulada en la misma y los requisitos de acceso

esa ley que requería un cambio de modelo según sus propias palabras palabras de la representante en este pleno

ustedes quieren restaurar aclárense porque su postura no es nada congruente pero además insisto la derogación

entrada en vigor inmediata de las condiciones reguladas en la ley de dos mil ocho habría que redactar una nueva ley en segundo lugar pensamos que las leyes en general no pueden ser modificadas y vueltas a modificar

el principio de seguridad jurídica exige responsabilidad

eztabaidatzen dugunean respecto a los puntos segundo y tercero

porque en este momento no hay dinero para crear ese fondo que pretenden ha quedado claro que las líneas rojas del gobierno serán acción social educación y sanidad que son además las partidas con mayor peso en el presupuesto y las que se deben mantener pero también somos conscientes de la situación actual y sabemos que no es posible crear ese fondo hay que ser rigurosos con el gasto y con las propuestas que se plantean máxime si suponen contraprestación económica

a las posibilidades financieras de las instituciones en estos momentos de crisis económica sostenida además la pretendida aplicación del fondo con carácter retroactivo plantea serios problemas jurídicos de difícil encaje legal azkenik legezbesteko laugarren puntuari dagokionez

bilduri puntu honi baiezko botoa ematea respecto a la enmienda del pp

euzko abertzaleak cree que es peligroso además de no ser cierto transmitir a la sociedad la existencia de fraude generalizado en los perceptores de ayudas sociales estamos de acuerdo en mejorar el funcionamiento de lanbide y así se recoge en la enmienda transaccional

en el caso que se demuestre su existencia pero flaco favor hacemos a la sociedad transmitiendo un mensaje incierto en el que se tacha a la mayoría de perceptores de ayudas

presidenta buenos días de nuevo yo quería empezar recordando que

recorta el gobierno de españa sino que también lo puede hacer y lo ha hecho en un pasado más o menos reciente el gobierno vasco esa es una realidad que a veces se obvia porque

de que es únicamente el gobierno de españa quien recorta y en los últimos tiempos ciertamente es así pero también el gobierno vasco

con las ayudas sociales y yo quería recordar que upyd

se opuso a todos esos recortes sociales impulsados en este caso por el grupo socialista y por el grupo popular la pasada legislatura

y en consecuencia nosotros nos reservamos la posibilidad de plantear una modificación legal de esta ley cuando lo consideremos oportuno desde luego

de ehb que no tiene sentido la derogación que ellos plantean y que esa derogación no tendría ningún tipo de repercusión efectiva

en todo caso puesto que nos consideramos un partido responsable que sabe tener en cuenta la situación económica en la que nos encontramos digo que en todo caso

actuales y teniendo en cuenta que el sistema de protección vasco es excepcional y que no tiene ningún parangón en ninguna parte de españa y que estamos hablando

y un presupuesto de más de cuatrocientos millónes de euros entendemos

lo prioritario es mantenerlo en sus términos pero perfeccionándolo en algunos

y nosotros pensamos que habría que tener básicamente en estos momentos tres prioridades por un lado perfeccionar y mejorar la inclusión laboral que realmente

empleabilidad de las personas se trata por lo tanto de poner a disposición de estos colectivos desfavorecidos las herramientas para que puedan volver al mercado de trabajo

posibles creo que este es un asunto prioritario en segundo lugar efectivamente como aquí se ha dicho mejorar la labor desarrollada por lanbide y mejorarla

incluso de primera mano las denuncias que viene recibiendo en los últimos tiempo el ararteko se están produciendo retrasos

existen obstáculos y dificultades en la entrega de la documentación necesaria existe cierto caos y por lo tanto este gobierno debería tener como prioridad

hasta ahora y en tercer lugar creo que también es prioritario instar

a no recortar las ayudas sociales del presupuesto del año dos mil trece como por otro lado nosotros venimos repitiendo en las últimas semanas antes que perjudicar a los más desfavorecidos se pueden hacer muchas otras cosas se pueden implementar otro tipo de políticas se pueden llevar a cabo otro tipo de actuaciones y también efectivamente actuaciones en la fiscalidad y nosotros esperamos

puedan llevarse a cabo cuanto antes lo cierto es que esto es lo que pensaba yo decir y es lo que

y vista la enmienda transaccional firmada entre el grupo nacionalistas vascos y el grupo socialistas vascos ciertamente es lo que básicamente recoge por lo tanto nosotros votaremos a favor de esa transaccional que han firmado ustedes

está el viejo asunto que reiteradamente nos trae la señora garrido como es el fraude en las ayudas sociales ya nos ha dicho que efectivamente en un futuro inmediato volverá a traer este asunto

a quedarse solo en esa reivindicación vamos a ver nosotros queremos que se cumpla nosotros queremos que funcionen los controles y nosotros queremos que las ayudas lleguen a las personas que realmente las necesitan lo que nosotros no estamos dispuestos es

peligroso que no compartimos en absoluto y que trata de vendernos la idea de que el fraude en las ayudas sociales es poco menos que generalizado

que no es así en absoluto creo que es un craso error tratar de estigmatizar

que es la más débil de la sociedad estos beneficiarios de ayudas sociales creo que por lo tanto es muy mala idea insistir permanentemente

perfeccionar y mejorar la inclusión laboral mejorar la labor desarrollada por lanbide y efectivamente comprometernos a que no haya nuevos recortes en las ayudas el verdadero fraude que existe en euskadi es el fraude fiscal eso sí es un asunto prioritario eso sí es algo absolutamente fundamental que deberíamos corregir pero no es un asunto

de una gravedad extraordinaria este supuesto fraude que ustedes plantean como generalizado porque no lo es

ni vamos a apoyar las enmiendas o iniciativas que planteen en ese asunto por lo tanto dicho lo dicho efectivamente nosotros votaremos a favor de la enmienda transaccional firmada por el grupo nacionalista y el grupo socialistas vascos

nolabait ha aumentado considerablemente el número de denuncias relacionadas con la renta de garantías y de ingresos

las suspensiones o las denegaciones se habla de europa

como si fuese la panacea de todo y en algunas cosas evidentemente están mejor

pero se habla de europa para hablar de la renta de garantía de ingresos pero no se habla de europa para hablar del número de desempleados y paradas y parados que existen en europa y que hoy tenemos en euskal herria y en esta comunidad autónoma vasca

en conveniencia a aquello que quiere defender en cada momento no es suficiente ni es ni tiene ningún sentido lo que está quedando claro para nosotros y para nosotras es que no hay voluntad como decía anteriormente

verdaderamente mal y eso nos preocupa porque cada vez hay más personas vulnerables cada vez hay más personas que no pueden acceder a tener una vivienda a tener

garantizada y no hay soluciones para todo eso y antes de acabar y defendiendo que

este parlamento debería dar paso y por supuesto el gobierno vasco debería de dar pasos

en todo ese tema y mejorar la situación de todas estas personas añadir también que los que delinquen

algunos van a la cárcel conocemos a muy pocos de esos del guante blanco que terminan yendo a la cárcel

el partido que impuso la amnistía fiscal que sabe muy bien cómo se cambian las leyes de un día para otro de cualquier manera

de cómo se deben hacer las cosas y de cómo se deben de plantear las propuestas

es necesario el control sí y acabo con estoy pero no de cualquier manera

también recibimos dinero público por lo que hacemos no creo que estaríamos dispuestos a que se nos fiscalizasen nuestra vida como se está fiscalizando hoy en día a algunas personas el control de las cuentas bancarias del gasto del móvil en electricidad suspensiones por haber hecho de rey mago sin ponerlo en conocimiento a lanbide

un poco de cuál es la situación triste grave que viven muchas personas en esta comunidad autónoma vasca eskerrik asko

presidenta se pretendía con la reforma de la ley cuatro barra dos mil once mejorar la gobernanza de nuestro sistema de garantía de ingresos tratando de hacer más sostenible dándole a su vez un sentido al ejercicio del doble derecho que la norma

esta reforma lo que defiende es trabajo y activación para quien puede tenerlo y obtenerlo y protección social y seguridad

la modificación legislativa estaba relacionada con una culminación de gran relevancia que se produjo en ese momento como era la transferencia

de las competencias en materia de políticas activas de empleo permitiendo unas posibilidades hasta entonces inexistentes

o de bienes económicos que puede tener o no se procedió a una modificación del requisito de empadronamiento y residencia efectiva del apartado b del artículo dieciséis pero

al municipio donde se hace la solicitud de prestación correspondiente

euskadi es la única comunidad donde los ciudadanos saben que tiene una cobertura garantizada de forma indefinida y a todos además se les integra en un sistema lanbide con lo que

se les garantiza la oportunidad de formarse para encontrar un trabajo en fin afrontamos ese debate lo explicamos en la cámara y lo explicamos

el sistema de garantía de protección vasco incluida la reforma es el más amplio

sino de muchos países europeos y aquí estamos hablando no de otros datos sino de las ayudas sociales por ejemplo en dinamarca y finlandia se piden cinco o siete años de empadronamiento en alemania

y miembros de la comunidad europea y en austria solo se perciben las prestaciones

por no decir del resto del estado donde cualquier ciudadano si no tiene el requisito de residencia legal no puede percibir la prestación y además está limitada en el tiempo lo que no queríamos es que ocurriera en euskadi lo que ocurría en aquel momento por ejemplo en aragón donde no se podía pagar rentas mínimas o como ocurría en cataluña donde

a los que no se le podía pagar porque no tenían recursos económicos para ello nosotros contamos en euskadi con un modelo afortunadamente lo hemos venido construyendo

con mucho consenso entre todos contando además con ese consenso pero que debemos de seguir trabajando en esa línea nosotros hemos sostenido políticas sociales siempre

sin recortar todo y es evidente que cuando en un país lo que se hace y se recorta es la sanidad la educación la dependencia las prestaciones la innovación

quiero dejar muy claro que mi grupo está completamente convencido

y hay que seguir trabajando también en la mejora y agilización del funcionamiento de lanbide señora garrido que no se haya incluido dentro de la enmienda lo referente al mecanismos de inspección y control no quiere decir porque sí se pusieron en marcha por lanbide y en coordinación también con la inspección de trabajo por eso es importante también estar informados a la finalización de cada periodo de sesiones

si queremos saber cual es la situación real en la que nos movemos en todo momento es de gran importancia por tanto también a juicio del grupo parlamentario socialista garantizar en los presupuestos del dos mil trece las ayudas sociales dada la dificultad de la situación que seguimos atravesando y atendiendo la especial vulnerabilidad

y como ya he indicado anteriormente haciendo las revisiones que procedan teniendo en cuenta las nuevas perspectivas de ingresos con las que podamos contar y reiterar que en mi grupo a partir de los nuevos datos que se están barajando en estos momentos dado que se están debatiendo nuevos ingresos y se puede acometer una reforma fiscal participará en un debate a fondo de ideas

sociales dentro del sistema vasco de garantías de ingresos y de inclusión social por ello y para ello el grupo parlamentario socialista votará a favor de la enmienda de transacción acordada

gracias señora presidenta bueno señor maneiro está muy bien esa apreciación a pesar de que ustedes no gobiernan en ninguna administración de que todos los gobiernos

realizar ajustes en este contexto económico en el que estamos

ya en reiteradas ocasiones últimamente lo están diciendo de forma como digo muy reiterada distintos miembros del ejecutivo el señor urkullu el señor erkoreka que vamos a tener que ajustar

por parte del grupo popular dónde están las prioridades del grupo nacionalista vasco a la hora de presentar esos presupuestos con esos ajustes y señor maneiro como estamos al comienzo de la legislatura y usted ya sabe que esta parlamentaria cuando

presentar un tema en esta cámara pues lo presenta sin ningún problema consideramos que el tema

de que las ayudas tienen que llegar a las personas que realmente lo necesitan y precisamente por eso para garantizar que las ayudas lleguen a las personas que realmente lo necesitan hay que

y es que no nos quedamos solos la pasada legislatura es que hay dos acuerdos en dos ocasiones suscribimos un acuerdo entre el partido socialista partido popular partido popular partido socialista que decía lo siguiente el parlamento vasco insta al gobierno vasco a definir en el plazo de tres meses y poner en marcha

de las prestaciones económicas previstas en la ley este acuerdo también

quince de marzo de dos mil doce por lo tanto no nos quedamos solos en la pasada legislatura en este tema entró el partido socialista que por otra parte señora sánchez no entiendo entonces donde está el problema si ustedes suscribieron ese artículo no entiendo qué inconveniente tenía en

hacer esa referencia en la enmienda que han firmado con el partido nacionalista vasco en cualquier caso son ustedes expertos en idas y venidas en sus posiciones no sé si esto obedece o es una muestra más de ello el no haber incorporado un acuerdo

cuando estaba en la oposición aquello de que algunos criminalizábamos la pobreza luego cambió no sé si por esas cosas que

ahora parece que ustedes los acuerdos a los que dio su conformidad la señora zabaleta pues no los consideran

de ello en cuanto al partido nacionalista vasco

han caído en ciertas incoherencias señora agerri no sé si también por eso del poder porque

la pasada legislativa y de forma bastantes efusiva fue el descenso del siete por ciento en la cuantía de la rgi y tengo entendido

urkullu que parece ya que se va convirtiendo en una tónica general cuando el partido socialista deja los gobiernos de que el escenario no erá

de la rgi esa cuantía que se disminuyó la pasada legislatura y que ustedes

y bienvenido sea que al final de alguna forma ustedes hayan dado el aval a una reforma

que entre otras cosas mejoraba el sistema de protección en nuestra comunidad autónoma

de la ley de garantía de ingresos y para la inclusión social como modificaciones

exigiendo más requisitos para el acceso a las prestaciones pero no solo eso sino verificando que luego se cumplían esos requisitos porque también fue la señora zabaleta la que suspendió creo recordar siete mil expedientes cuando revisó

bienvenido no sé si será por eso de que están en el gobierno pero bienvenido sea y en cuanto al acuerdo que han alcanzado pues decir que nos vamos a abstener sé que han incorporado alguna cuestión que nosotros planteábamos en la enmienda

electoral pues la palabra control del fraude de las ayudas sociales no sé si porque los decíamos algún otro grupo

electoral el partido nacionalista vasco no quería quedarse fuera y lo sostuvo también están ahí las palabras del propio azkuna cuando viendo que tuvo que arbitrar

mecanismos de control de seguimiento e inspección en las ayudas sociales nada más y muchas gracias eskerrik asko garrido andrea

y que todos los perceptores de ayudas sociales o que la inmensa mayoría actúan de forma fraudulenta para la obtención de las ayudas sociales porque no es verdad porque eso no es verdad y flaco favor estamos haciendo a la sociedad haciendo calar ese mensaje eta gero

es necesaria una mayor responsabilidad de todos los grupos y no puede ser que se vaya cambiando la ley de acuerdo al color del gobierno o del partido que esté

profundamente obsesionada con el hecho de que upyd todavía no gobierne en ninguna parte de españa yo creo que si siguen ustedes por el camino que van

en breve no van a gobernar en ninguna parte de españa con lo cual es muy probable también que haya bastantes menos recortes sociales que los que se han venido impulsando por parte especialmente del gobierno de españa yo señora garrido no he dicho que todos los gobiernos tienen que recortar yo he dicho que

el gobierno vasco eso es lo que yo he dicho y nosotros nos hemos opuesto a ese tipo de recortes sociales impulsados bien

o bien desde el gobierno central y lo seguiremos haciendo en el futuro porque efectivamente antes que impulsar recortes sociales se pueden impulsar otro tipo de políticas y se puede

se pueden impulsar reformas fiscales se puede luchar más y mejor contra el fraude fiscal o se puede reducir drásticamente el número de empresas públicas semipublicas

o chiringuitos que existen en euskadi lo prioritario por lo tanto es impulsar ese tipo de políticas

de impulsar nuevos recortes sociales que en ningún caso contarán con nuestro apoyo

se están quedando reiteradamente solos en la pretensión de estigmatizar o criminalizar

de las ayudas sociales esa es la realidad tantas veces traen el asunto a esta cámara que efectivamente es evidente que son ustedes los que están criminalizando y estigmatizando a los beneficiarios de las ayudas sociales

en las ayudas sociales y todos los representantes en esta cámara queremos que se acabe con ese fraude pero lo que no aceptamos es tratar de trasladar la idea

de euskadi o el problema fundamental de euskadi el fraude que existe en euskadi es el fraude fiscal ese es el fraude que todos nosotros deberíamos acabar con él eso sí y si de si hay fraude en las ayudas sociales lógicamente hay que impulsar

en aceptar la idea de que ese fraude es generalizado y mucho menos que sea el problema fundamental que tiene euskadi como usted quiere

hauxe berea ekiditeko señorías los socialistas queremos en este pleno ofrecer una solución a quienes se puedan ver afectados

queremos que se utilicen nuestras competencias para evitar un gasto añadido injusto y que afecta al derecho a la protección pública de la salud porque aquí en euskadi lo podemos hacer tenemos instrumentos para evitar esta injusticia y queremos el compromiso de todos también de nuestro gobierno para impedirlo

creemos profundamente en la capacidad que tenemos en euskadi para crear un sistema público de bienestar y cohesión social dotado con recursos suficientes

para impedir que nuestros mayores a quienes se congela y no se revaloriza las pensiones que ya han cotizado para acceder a la medicación

creemos que tenemos herramientas para evitar que sean los enfermos los que paradójicamente tengan problemas de acceso

por eso nuestra iniciativa no es una mera declaración de oposición a las medidas adoptadas por el gobierno de españa es una medida a favor del servicio público de protección a la salud de los ciudadanos vascos por eso esta propuesta no ser queda en una encomienda genérica al gobierno vasco es un compromiso de la cámara

que nos anuncian recortado queremos blindar este sistema público en este sentido pedimos

este sistema de salud que garantice la universalidad que sea público y gratuito que sea de calidad y que para ello utilice todos los instrumentos jurídicos y el primer reto jurídico es la defensa del decreto aprobado por el anterior ejecutivo en el uso de sus competencias para garantizar este derecho precisamente

ya nos dijo que teníamos razón cuando defendimos el derecho a la asistencia a los inmigrantes irregulares y ahora toca que el gobierno se vuelque en impedir el copago nuestro grupo está convencido de que nos asiste la razón

no podemos ser insumisos debemos acatar la sentencia eso sí sin perjuicio de nuestra capacidad para utilizar otros instrumentos en nuestra mano en breve tendremos que discutir los presupuestos pues bien

incluya o que se destaque un fondo de compensación para los colectivos que se vean afectados por la imposición de esta medida un fondo cuyo costo puede ser compartido con medidas fiscales

por este gasto añadido porque creemos que todas las instituciones tenemos que estar implicadas en este objetivo y todos tenemos capacidad competencial para hacerlo y añadimos una última consideración que el coste total para las arcas públicas vascas

esta fórmula del descuento ya la hemos aplicado en otras cuestiones que hemos considerado estratégicas para euskadi de hecho lo hacemos para avanzar en los trabajos del tren de alta velocidad

para la salud es que hay algo más estratégico que el derecho a la protección de la salud por otra parte la cuantía no es elevada que esa es la mayor

sin conseguir a cambio un gran beneficio económico el anterior consejero de sanidad rafael bengoa ya adelantó que las distintas fórmulas de copago

supondrían un ahorro que no un gasto para las arcas públicas un ahorro de treinta y tres millónes de euros treinta y tres millónes de euros en unos presupuestos superiores a los tres mil pero alertó

podrían ser superiores al ahorro obtenido por no hablar del coste real

el de la salud de los vascos el de quienes se lo piensen tengan que pensárselo dos veces o elegir

que los hay porque decir que dieciocho euros al mes no son nada que eso es mínimo que se lo pueden quitar de cafés es algo propio

en el que se vive que no están al tanto de la dramática situación por la que están pasando tantas familias

volver a acoger a hijos y a nietos y que les dan de comer con sus propias pensiones

de la realidad social o por tener intenciones más oscuras y de seguir así no sé si este tipo de decisiones acabará algún día en ese modelo a la japonesa

opta por recomendar a los mayores que se mueran cuanto antes porque una población muy longeva es una carga muy importante para la sociedad

también lo advirtió el consejero bengoa el copago aparte del daño que causa a los colectivos afectados lanza un mensaje profundamente negativo

también para aquellos que hoy gozan de buena salud y que no se dan por aludidos se les está diciendo se está mandando un mensaje en el que se dice que el paciente

pues no los socialistas nos negamos apostamos naturalmente por medidas de eficiencia en la gestión esas que en la pasada legislatura permitieron atender

y sin embargo con presupuestos congelados o menguantes tales medidas apuestan por recetar medicinas genéricas por las subastas de medicamentos para alcanzar el mejor precio o por instaurar y continuar con la estrategia de atención a crónicos estas son las medidas con las que se pueden permitir ahorros y destinar esos ahorros

a hacer un servicio mejor y a hacer en definitiva una sanidad sostenible por eso nos oponemos al copago farmacéutico al del transporte y al

con este mismo argumento nos defendimos ante el constitucional para hacer valer el derecho a la atención sanitaria de los inmigrantes ilegales porque creemos en sus derechos a la protección

y porque pensábamos que la decisión del gobierno de españa no ahorra

recupero lo que dijo en diciembre el constitucional a la vez que defendía el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de los inmigrantes sin papeles señalaba la convivencia de evitar riesgos para la salud al conjunto de la sociedad

que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado y esto es lo que venimos defendiendo aquí

considerara que hay cuestiones o que por cuestiones competenciales

de rajoy hacemos valer otras competencias las de compensación las de asistencia social las fiscales porque en definitiva que el gobierno vasco

que siga defendiendo el autogobierno pero aplicándolo en defensa del estado de bienestar para hacer que sea verdad y que sea realidad

que más autogobierno signifique más bienestar que no haya excusas de dificultades presupuestarias dificultades que no habría por cierto

hace ya tres años por tanto queremos que hoy blindemos con medidas concretas el derecho a la protección pública de una sanidad universal gratuita